gure komunikabideetan gure egunkarietan horrelako titularrak irakurtzera cuando los jóvenes acceden al empleo ganan un veinticuatro por ciento menos

el primer sueldo que ingresan los jóvenes vascos apenas alcanza los novecientos euros

o la juventud vasca debería cobrar el doble para poder independizarse en solitario

adierazitakoa todo esto no es suficiente

con un gran pacto de país para abordar con éxito el reto de mejorar nuestras tasas de natalidad tan necesarias para asegurar nuestras pensiones

nuestras empresas fuente irekia

no compartimos ese planteamiento principalmente porque pone las necesidades de la economía y de los mercados en el centro y no a las personas pero es que además tampoco se sostiene por sí mismo si no explíqueme para qué queremos tener más hijos e hijas

para la que no hay trabajo aquí o el que hay es tan precario que tienen que marcharse afuera para poder desarrollar un proyecto de vida digno hemos nacido para vivir

se ponen en valor acciones específicas de las políticas de juventud centradas en inclusión social y la capacitación de los jóvenes incluyendo acceso a los derechos y a la participación política

y en el último estudio que data de dos mil quince sobre valor del trabajo juvenil en la unión europea

se ha puesto de manifiesto el valor del trabajo juvenil para los jóvenes en diferentes aspectos de sus vidas

y los enfoques de calidad del trabajo juvenil informes que hablan del cambio de paradigma y que recogen una serie de recomendaciones sobre las que plantear políticas de inserción laboral de la juventud y de creación de puestos de trabajo que atiendan a las características de este sector poblacional al contrario y no al revés como se está haciendo hasta ahora y cómo se vienen diseñando dichas políticas eta zentzu berean cesek euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetarako

con el acuerdo de hoy fortalecemos el cambio de concepción iniciado en este sentido tras el acuerdo sobre el plan estratégico de empleo dos mil diecisiete veinte de la semana

akordio zabal honetan y respecto a la ley de juventud también nos congratulamos

puesto que el gobierno no la recogía en su calendario legislativo por cierto haciendo caso omiso de lo aprobado en el dictamen de la ponencia de juventud de la legislatura pasada donde recomendaba el próximo gobierno en su calendario legislativo recogiese la ley de juventud y este gobierno hizo caso omiso a lo mismo pero bueno gracias son cosas del pasado gracias al trabajo y al

hemos conseguido que por fin el gobierno se ponga las pilas y vaya a traer una ley de juventud a esta cámara va a tener que

y lo que a nuestro entender es más importante y así queda recogido también en el acuerdo de hoy introduciendo medidas cualitativas para la emancipación de las personas jóvenes

en los presupuestos recursos suficientes para su materialización para nosotros y nosotras esto es importante ya que es como he dicho una ley que el gobierno

políticos va a tener que traer a la cámara y que a través del acuerdo de hoy los grupos que forman el gobierno se suman a dicha petición y además en los términos anteriormente citados

un buen acuerdo otro acuerdo positivo por lo tanto en el día de hoy eta noski lanbideren lan prospektiboa tresna nagusi giza kokatzea bi mila hamazazpi bi mila hogei

hartzen duzuen benetan porque es

que quieran ustedes iniciar la tramitación de la ley ahora antes del treinta de julio cuando en marzo de dos mil diecisiete

hace catorce meses exactamente se pidió al gobierno que trajera al parlamento la ley de juventud antes de finalizar el año dos mil diecisiete es decir hace cinco meses

a nuestra generación se nos decía que estudiáramos para poder tener un futuro digno y estudiamos y a pesar de ello tal como decía juventud sin futuro hoy en día gran parte de la juventud se encuentra

y en ello seguimos luchando por un empleo digno por un futuro digno con el cual poder realizarnos y vivir tranquilamente porque la generación más preparada que hemos tenido nunca

en nuestra comunidad autónoma de euskadi se sitúa en el veintisiete coma siete por ciento y son cifras que son realmente escandalosas ya he dicho en esta tribuna y también se lo he dicho a la señora artolazabal

de recesión económica aumentan en todos los sectores de la población el número de personas desempleadas y no hay ninguna duda al respecto pero para la juventud especialmente

en primer lugar somos el primer objetivo de los recortes en los empleos y en segundo lugar nuestra transición del sistema educativo al mercado de trabajo se convierte en una tarea casi imposible de llevar a cabo y es que a la vez que hablamos de la generación mejor preparada de la historia de euskadi no se nos ofrece ningún marco que consiga canalizar dicho conocimiento y esto provoca auténtica frustración en tantas y tantas personas jóvenes pero es que además por otra parte y desde un punto de vista social a nivel general es un desperdicio total

la nueva situación de la juventud por lo tanto se caracteriza por la dificultad de la transición desde la vida académica a la profesional lo que además conlleva un retraso en la emancipación y sobre ese sentido lamentablemente los datos hablan por sí solos ya lo he dicho más de una vez también solo el cuarenta y ocho por ciento de las personas jóvenes en euskadi se ha emancipado

treinta años a pesar de que la propia juventud vasca cree que la edad ideal para ello son los veinticuatro miren en europa la edad media para independizarse son los veintiséis años

hasta los veintiuno años y solo el dieciséis por ciento de los mismos viven con su padres

pues con este panorama señora artolazabal vino usted a este parlamento a presentar un plan joven muy parecido al de hace cuatro años en el que solo se superaron el cincuenta por ciento de los indicadores establecidos según el propio gobierno vasco decía el señor estarrona que

pero es que además los indicadores cuantitativos que aparecen en el mismo no están cuantificados y nos viene usted a presentar un plan sin ningún repito objetivo cuantificado que permita ver

si se ha cumplido o no el objetivo y el cuantificar objetivos señora artolazabal es crucial a la hora de saber si la estrategia ha funcionado o no

permítame leer algunos de los objetivos de este cuarto plan de juventud

se realizará en base a los indicadores definidos un objetivo es más jóvenes con empleo de calidad objetivo que compartimos desde elkarrekin podemos y los indicadores para ver si se ha cumplido o no son los números de jóvenes contratados

el número de jóvenes que han retornado a la comunidad autónoma de euskadi a través de los programas impulsados

lo que pasa es que no sabemos qué meta se pone el gobierno

de debatir en torno a ello y para poder evaluar el cumplimiento de este objetivo o no tenemos que saber que meta se pone el gobierno otro objetivo mejora

número de empresas que han acogido jornadas formativas en sus centros cuántos jóvenes señora artolazabal

con cuál se queda usted señora artolazabal otro objetivo más personas jóvenes emprendedoras indicadores número de empresas creadas por personas jóvenes

cuántas personas jóvenes emprendedoras señora artolazabal los que usted considere los que su gobierno considere cómo sabrá este parlamento y la sociedad en general si el cuarto plan de juventud se ha cumplido o no debe creer lo que su gobierno diga sin cuestionarlo

un documento titulado orientaciones para la elaboración de los planes de gobierno por los departamentos donde se dice literalmente que

existentes los recursos económicos constituyen el mayor condicionante para abordar las políticas públicas la incorporación de la perspectiva económica resulta consustancial a la planificación dotándole de sentido una planificación desligada de una perspectiva económica real

pues bien señora artolazabal olvídese por favor de planes insustanciales y de meros ejercicios de buena voluntad le pido por favor que no venga más a este parlamento a presentar planes sin una planificación económica real

o con la estrategia vasca para personas sin hogar casi la mitad de los jóvenes vascos creen que el año próximo no podrán vivir

porque entre los jóvenes trabajadores impera el desempleo el empleo precario y la baja remuneración pero la precarización de la juventud y su falta de oportunidades

la falta de oportunidades de ocio saludables la falta de una visión de la justicia juvenil como algo que vaya más allá de la delincuencia la inversión en programas de juventud

como alguna vez ya le he comentado en fin que ser joven

no favorecen sino que actualmente entorpecen nuestra capacidad de desarrollar vidas plenas en el momento que elegimos desarrollarlas creemos que eso tiene que cambiar

con mirada larga y paso corto por ello abordemos de una vez la ley de juventud aprovechando lo realizado hasta el momento los instrumentos existentes

un marco potente un marco referencial que nos permita dar a nuestras personas jóvenes unas soluciones dignas luchemos por un futuro en el que merezca la pena quedarse en euskadi un futuro digno

pero que también sea capaz de regular y de mirar mucho más allá de este señora artolazabal la forma de comenzar es dejar de hablar
y comenzar a hacer así que póngase las pilas de una vez por favor eskerrik asko

gracias señora presidenta buenos días a todas

de las intervenciones que se produjeron en el año pasado con ocasión de un debate similar

cita de que los jóvenes son el presente y el futuro tan solo les espera

de los discursos que realizamos creo que etiquetar a los jóvenes como el futuro es una forma de relegarles

para el presente las personas jóvenes sin embargo sí las tienen y exigen a las administraciones públicas respuestas concretas

los que tienen actualmente por tanto y aquellos otros que sienten como amenazas para su futuro

la convivencia justa y fácil y pacífica o el sostenimiento ambiental

jóvenes al final es una etapa de la vida en la que experimentamos tantos cambios

ese espíritu por el tiempo que sea la actitud no tiene que ver con la edad pero sí que es verdad que por muy jóvenes que seamos hay momentos que ya pasaron

y aun suponiendo que pudiéramos el que quiera hacerlo tiene que saber qué ha de atenerse a las consecuencias porque la situación de los

es una situación precaria si puedes volver atrás y ser joven y lo haces hay que ponerse en el lugar de una persona como ellos

con unas ganas abrumadoras de acceder al mercado laboral y que vea que no lo consigue o que quien lo consigue

en el empleo en el salario y en la vida creo que a muchos y a muchas de nosotras que estamos convencidas de nuestra capacidad de aleccionar y resolver y atender en todo a nuestros jóvenes nos falta saber y vivir realmente lo que padecen con independencia de la edad de aquellas personas que hemos intervenido

lo mismo podemos decir que los datos nos dicen que a lo mejor

vasca no es la más fácil yo no voy a abundar en los datos porque se han reiterado en la primera de las intervenciones también en la segunda voy a señalar que nosotras

que el desempleo es un problema de la juventud vasca que uno de cada diez jóvenes es pluriempleado que la temporalidad

con creces la media europea y que se ha producido un notable incremento del empleo parcial solo

y las jóvenes ocupados afirma tener un trabajo relacionado con su formación

menor de treinta años percibe riesgo de pérdida o precarización de su empleo aumenta el porcentaje de quienes llevan parados más de un año parado de larga duración en los y las jóvenes y la edad de emancipación se ha subrayado en esta institución más de una vez es de treinta años muy superior a la media europea esta es la realidad y este es el análisis aquí no caben vaguedades y lo habéis subrayado varios de vosotros estamos hablando de un colectivo

que tienen que ver cómo se les reconoce no se les reconoce la categoría profesional

solo por ser jóvenes las personas jóvenes de nuestro país ven perplejos hoy en día cómo hemos montado un sistema entre todos y todas no solo aquí sino también fuera

por cuestiones de edad en el mercado laboral por tanto yo posicionamiento compartido yo creo que del que parte la base de la moción presentada

de mejorar de pedir la mejora de las condiciones laborales en la juventud reducir

y parcialidad en los contratos y la inclusión laboral de jóvenes en riesgo de exclusión por ello queremos decir que no

apostamos por mejorar sí los contratos en prácticas los de formación y aprendizaje para evitar su uso fraudulento y que se retome el contrato de relevo

sirve de sustitución natural de la persona que se va a jubilar lo he dicho antes creo que en varias ocasiones si queremos acabar con todos estos mitos o rémoras que afectan a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes

fraudes entre ellos para acabar con ellos debemos de abordar cuál es el reto prioritario la emancipación y vida autónoma

y que afectan a todas las políticas de juventud que es el proyecto de ley de juventud hablamos también de propuestas concretas y hablamos de propuestas concretas de vivienda como ha hecho el gobierno vasco con las ayudas al alquiler yo entiendo que ese es el completo por una parte que es lo que se ha intentado plasmar con mayor o menor acierto en la enmienda o propuesta transaccional

íntegra no solo trasversal por afrontar los retos

esas dos cuestiones fundamentales para la emancipación y vida autónoma empleo y vivienda vivienda se ha hecho recientemente y empleo a través de esta

creemos que es posible y hacerlo como han explicado y se desarrolla también en la enmienda transaccional abordando esos nuevos retos desde el paradigma de sentar las políticas públicas en esa visión

como cuantitativa y desde el trabajo prospectivo de seguimiento y de control antes hemos

con todos los intervinientes la gravedad de la situación de la juventud vasca hoy además compartimos una moción que creo que hace frente con mayor o menor acierto

haber sido más en un sentido o más en otro esos problemas con la mayor celeridad posible y sobre todo con el mayor consenso

podía incluir esas medidas concretas desde esa visión prospectiva que todos y todas compartimos es cierto que había que atender también a los colectivos más excluidos como decía en el segundo punto y es cierto también que había que traer la ley de juventud a la mayor

nosotros presentamos una ley de juventud allá por el dos mil diez

va a ser hecho y contará desde luego con el apoyo del grupo socialista muchas gracias eskerrik asko romero andrea

en los últimos plenos ordinarios hemos debatido en varias ocasiones sobre las actividades y los planes que nos presenta el departamento de empleo política sociales y juventud que dirige la señora artolazabal

el conjunto de los grupos hacia una serie de puntualizaciones sobre la estrategia general de empleo que todos los grupos entendieron que se quedaba un poquito corta y que era necesario

nos trae un debate similar parecido pero centrado en otro colectivo que es el de los jóvenes cuando la señora artolazabal nos presentó el cuarto plan de juventud

al comienzo del plan ella misma fue desgranándola dato por dato una situación bastante preocupante hoy tenemos datos nuevos se han dado muchos pero hoy tenemos unos datos nuevos esos datos que la señora artolazabal nos facilitó en la comisión correspondían al dos mil diecisiete y hoy tenemos

el informe laboral de euskadi elaborado por la señora de la rica correspondiente al primer trimestre del dos mil dieciocho y los datos por desgracia no son mejores

con los de la epa porque son parámetros diferentes pero los datos no son

se sitúa en el once coma ocho por ciento la de los jóvenes se eleva hasta el veintisiete coma siete por ciento un dato tremendo un dato demoledor

superaba el cincuenta por ciento o rondaba el cincuenta por ciento de los desempleados entre los jóvenes pero también es cierto que antes de la crisis en el dos mil seis el cincuenta y cuatro de cada cien jóvenes que querían trabajar

de los jóvenes están trabajando el resto de los datos los salarios más bajos

que ronda de media el veinte por ciento es otro dato francamente abrumador y preocupante una concentración del empleo

entre los jóvenes el índice de temporalidad es mucho más elevado que entre otros colectivos luego la situación es mala cuando se nos presenta este plan y

se presentaba la estrategia general de empleo y las soluciones a juicio del acuerdo al que hemos llegado todos los grupos incluidos los que apoyan al gobierno la solución que propuso el gobierno pues eran cortas flojas o necesitaban de complementos y por eso en el asunto de hoy hay un acuerdo de los cinco grupos parlamentarios vamos a centrarlo en dos cuestiones por un lado

siento que no le interese el tema señora artolazabal por un lado en el tema de los contratos de relevo

la edad de jubilación los resultados como ha dicho el señor estarrona y ha traído muy bien a este debate y lo trajo en la interpelación que le hizo al señora artolazabal los datos son demoledores son espanto es un despilfarro es decir los planes están pero nadie los utiliza algo pasa y la medida que nos propone la señora artolazabal es continuar con esos mismos planes pues

y que algo habrá que hacer y algo habrá que hacer también para que el empleo que encuentren los jóvenes sea también un empleo de calidad con unos salarios dignos evidentemente

tener o percibir el mismo salario que esa persona pero tampoco podemos permitir que los salarios no sean dignos y que el empleo se convierta empleo precario todos los grupos le hemos insistido además en el mismo acuerdo en que el instrumento fundamental que tiene para llevar a cabo esta función es lanbide un instrumento que si bien la semana pasada

pasar lanbide por el taller y que hiciera una serie de arreglos de chapa y pintura y le recomendábamos que cambiara el motor al vehículo para que pudiera rendir al cien por ciento

en las estrategias de las personas que trabajan para lanbide y que es un cambio impuesto porque los trabajadores no lo admiten no lo entiende y lo discuten y por eso están yendo

huelga entendemos que ese cambio de motor efectivamente la señora consejera lo ha hecho y donde tenía que poner un motor nuevo nos ha colocado el de una

ese instrumento es fundamental a tiempo está señora artolazabal volvemos a tenderle la mano desde el grupo popular para que esa reforma sea efectiva y consiga los fines que la sociedad vasca necesita el último punto del acuerdo

es instar al gobierno a que nos vuelva a traer la ley de juventud se lo pedimos en marzo del año pasado desoyó ese mandato nos dijo que no tenían tiempo cuando quieren sí tienen tiempo no hay más que deslizar un borrador de una norma que se está tramitando a los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno lo traen como

no lo hicieron entonces y hoy nos dicen que antes de junio

siguiendo los trámites necesarios por el gobierno confiamos es un eufemismo por supuesto confiamos en que cumplan ese objetivo que

un texto al que poder hacer aportaciones y que podamos apoyar y aprobar con el máximo consenso posible y que afecte
a la juventud de este país muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

azken finean señor ruiz de arbulo le decía a la señora artolazabal que si no le interesaba el tema

es un largo etcétera que decía usted señora gurrutxaga frustrazioa

que no cuantifica cómo lograr el cumplimiento de dichos objetivos del plan

leía antes un documento presentado por lehendakaritza en dos mil doce

y dice el documento la incorporación de la perspectiva económica resulta consustancial a la planificación dotándole de sentido una planificación desligada de una perspectiva económica real no pasaría de un mero ejercicio de buena voluntad es que eso no ha pasado solo con el cuarto plan de juventud señora gurrutxaga

inclusión de la señora artolazabal ha pasado con la estrategia vasca para personas sin hogar de la señora artolazabal

es que le estamos dando vía libre a que se hagan las cosas mal

para nuestra juventud y eso se consigue en gran parte no solo pero en gran parte con que la señora artolazabal haga las cosas bien no que haga las cosas mal y no le tenemos que dar vía libre para presentar vaguedades como ha estado presentando

y sin ver cómo evaluar el cumplimiento de esos objetivos o no y buenas voluntades en este parlamento y repito la señora artolazabal aquí ahora no presente hablando de juventud lleva ya más de año y medio en el gobierno

porque si no como siga así como sigamos avanzando así

socialista de euskadi como partidos que sustentan al gobierno quienes como han hecho la proposición de ley para la reforman de la rgi

la proposición de ley para la ley de juventud de euskadi y eso no lo queremos queremos que lo haga el gobierno como debe hacerlo eskerrik asko

desde el escaño en primer lugar lo más importante yo creo que sí es un buen acuerdo y hay que saber calibrar

en una perspectiva global que se dio también la semana pasada con respecto a empleo yo creo que en ese sentido iba la intervención del señor estarrona al que agradezco la disposición para llegar a ese acuerdo con los dos grupos con el

en los que hemos estado hablando porque esa es la cuestión con la estrategia de empleo nadie se mostró en contra pero es cierto que esa estrategia junto con el plan

como solicitaba el señor estarrona con medidas de choque dentro de ese plan y con medidas

así como con la presentación de la ley de juventud que todos compartirnos se haga a la mayor brevedad posible lo he dicho

se creen que por hablar mucho de ellos eso va a ser posible nosotros nos dimos cuenta que no presentamos la ley de juventud no salió presentamos también en la anterior legislatura proyectos tampoco fuimos apoyados pero por eso no vamos a decir que las personas apoyaron no han hecho ahora lo correcto cuando hemos consensuado en esta cámara mayoritariamente traer esa ley de juventud y debatirlo por lo tanto porque llegue tarde bien está lo que bien acaba muchísimas gracias a las personas que van a hacer posible ahora todas esa ley de juventud y en fin

la del resto del estado es tierra quemada sino propuestas concretas desde el punto de vista integral y desde el punto de vista particular muchas gracias a todos los que lo han hecho posible

decía eduardo galeano en su libro patas arriba que

el mundo trata a los niños pobres como si fueran basura el mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero

los tiene bien atados a la pata del televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera

tienen los niños que consiguen ser niños según el informe del estado de la infancia

si continúan las tendencias actuales sesenta y nueve millónes de niñas y niños morirán debido a causas evitables ciento sesenta y siete millónes de niñas y niños

siendo aun niñas en dos mil treinta fecha límite para los objetivos de desarrollo sostenible a menos que el mundo concentre sus esfuerzos en la situación de la infancia más vulnerable en enero de dos mil dieciséis la agencia de inteligencia policial europol estimaba que unos diez mil niños habían desaparecido al cruzar las fronteras europeas

que tomemos conciencia de la realidad y además de que en esa realidad niñas niños y adolescentes son ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad

y adolescentes y se toman decisiones a nivel de políticas públicas

una cosa tan importante a la máxima representante de este gobierno las niñas niños y adolescentes a menudo son invisibilizados en la agenda política y también en los medios

la infancia siempre ha sido subestimada por el mundo adulto y como plantea el jurista argentino garcía méndez

tienes existencia pero por lo que no puedes no sabes no debes o no eres capaz de hacer machaconamente desde las políticas públicas se reproduce el paternalismo y el autoritarismo que se critica en otros machaconamente el mundo adulto se considera con derecho a la representación absoluta de la voz las necesidades y los deseos de niñas niños y adolescentes pero sin permitirles participar como esa premisa del despotismo ilustrado que decía todo para el pueblo pero sin el pueblo

seguimos atrapadas en conceptos como menores sin considerar la infancia y adolescencia en su globalidad y como ciudadanía de pleno derecho lo décimos

pero no es un acto inocente la política institucional actual reproduce y recrudece la invisibilidad y el adultocentrismo y lo hace por ejemplo

de niñas niños y adolescentes en todas las políticas públicas que es lo que hoy nos trae reproduce la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia cuando no impulsa políticas claras y decididas para que las empresas sean corresponsables y tomen medidas concretas para la conciliación que permita un mayor y mejor desarrollo de la infancia pone en riesgo la cohesión la igualdad y los derechos de todas las niñas niños y adolescentes

pone en tela de juicio los derechos que asisten a todas las personas menores de edad en el mundo con unas declaraciones como las vertidas por la máxima responsable de este ámbito señora artolazabal este pasado domingo y que van contra la mismísima convención de los derechos del niño y la niña ha leído usted la convención háganos el favor

lo aventurado de sus declaraciones la convención recuerdo de las naciones unidas define como niño o niña a toda persona menor de dieciocho años usted ha dejado caer

y esto es muy grave porque si esta es la visión del gobierno sobre cómo se ha de proteger a la infancia

no se justifica que tengan derechos sus derechos y en el fondo también lo que hoy traemos aquí lo reconoce en la protección de nuestra normativa además de la citada convención de derechos del niño firmada y ratificada por el gobierno del estado

abro comillas la avalancha de menas no es un problema social si no de inmigración

está por un lado instalando una idea de avalancha que además de absurda es inhumana y por otro lado plantea sin decirlo que los adolescentes que vienen con quince o dieciséis años ya no son niños y deben ser tratados como adultos

de su cargo yo entiendo que a los partidos que sustentan al gobierno a los partidos que quieren hacer de este país un lugar amigable con la infancia les parece que esto no es apropiado es una insinuación irresponsable repleta de una carga discriminatoria estigmatizante y vulneradora de derechos fundamentales es totalmente de la máxima representante de las políticas sectoriales de infancia y además añade un disparate que en el ámbito de la infancia y la adolescencia está ampliamente superado desde hace años prioriza la condición de inmigrante sobre la condición de la infancia pero luego abandera en la necesidad de proteger a la familia en grandes titulares vacios como algo que nos tiene acostumbrada

porque hoy tenemos un buen acuerdo vuelvo al tema vuelvo a lo positivo y al paso adelante que hoy damos aprobando esta proposición no de ley

llegando a justificarla en ocasiones y para que vean que no hablo en abstracto voy a dar algunos datos las cifras sobre pobreza desigualdad y violencia y el fenómeno denominado infantilización de la pobreza

por hacer para que niñas niños y adolescentes ocupen en la sociedad y en las políticas públicas el lugar que les corresponde los datos confirman que en euskadi no estamos libres de este fenómeno

y en las oportunidades de niñas niños y adolescentes o mejor decir en la falta de oportunidades en el futuro y por consiguiente está comprometiendo el proyecto de una sociedad igualitaria

aspiramos la pobreza infantil siendo un concepto parcial que ya he dicho en muchas ocasiones aumenta y lo aumenta

en mayor proporción que para el resto de la población un nueve por ciento de los niños y las niñas del país vasco viven en situación severa un nueve por ciento esta tasa ha aumentado en euskadi en cinco puntos porcentuales desde el año dos mil diez y es superior a la correspondiente al conjunto de la población

medida por el índice gini ha pasado de veinticinco coma seis puntos a casi veintiocho las mayores tasas de pobreza infantil se

y de origen extranjero estos datos económicos tienen con relato claro en sus proyectos de vida y en el acceso a sus derechos en el sistema educativo existe una gran brecha de rendimiento escolar

uno coma dos veces superior a la de origen extranjero y hay mucho muchísimo por hacer también

una preocupación y una prioridad y no solo entre comillas cuando las papas queman porque además de adultocéntrica nuestra sociedad patriarcal también hay que nombrar que genera desigualdad a las mujeres y en los hombres y ejerce violencia hacia las mujeres por el mero hecho de serlo también

en todas las políticas en las sectoriales y en las universales y compartirla con el principio de interés superior de niñas niños y adolescentes en primer lugar

están expuestas a situaciones de doble discriminación pero además porque la protección

solamente sobre las mujeres de hecho los fenómenos de infantilización

son fenómenos estrechamente ligados y consecuencia directa de una desigualdad histórica y de una falta de corresponsabilidad social en el cuidado de quien lo necesita

pero señoras y señores las niñas y los niños y los adolescentes son el presente son hoy ciudadanas y ciudadanos de primera no ganarán derechos cuando cumplan los dieciocho años ya los tienen

de políticas y medidas especiales para su protección y para que esos derechos los puedan ejercer plenamente asegurando su futuro en conclusión tenemos un presente con indicadores altamente preocupantes es necesario que el gobierno que las políticas públicas a todos los niveles y en todos los ámbitos intervengan de forma decidida para revertir

y promuevan de verdad el bienestar de toda la infancia y la adolescencia en euskadi de la que nace aquí y de la que aquí vive lo dice

la consideración del interés superior del menor conlleva a ponderar adecuadamente las necesidades del niño implica garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la convención

ello implica que siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño o a una niña el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación

en esa criatura para cumplir con lo establecido por las normas y sobre todo con el objetivo de avanzar en una sociedad que asegure el bienestar de toda la infancia y la adolescencia y las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de todos las políticas públicas y todas las actuaciones de la administración pública habrán de incorporar este principio habrán de mantener un equilibrio adecuado entre las políticas universales destinadas a promover el bienestar de los niños y los enfoques específicos encaminados a apoyar a los más desfavorecidos es por todo esto que hoy traemos esta iniciativa al parlamento

hoy estamos dando un paso adelante creo que debemos

hoy acordamos incorporar el principio del interés superior del niño y la niña de forma transversal según establecen las normas en todas las políticas públicas y actuaciones de la administración pública

con una mirada específica además a la violencia sobre ellas quiero agradecer la generosidad de los partidos que van a apoyar esta transacción y la disposición para dar pasos adelante y en concreto agradecer la generosidad de eh bildu y del partido popular por alcanzar la transacción y la disposición

creo que hoy damos un paso de avance para la protección de la infancia en euskadi esperemos seguir trabajando desde la responsabilidad y la voluntad de dar pasos hacia delante hacia atrás ni para coger impulso besterik ez mila esker

argi dago ez duela akordio osoan ez dagoela poco que añadir a lo señalado por la señora guanche creo que ha hecho una exposición exhaustiva sobre el contenido de la iniciativa y el propósito de la iniciativa en relación a incorporar el principio de interés del menor en todas las

pública atendiendo a las recomendaciones del ararteko en este sentido hay que citar el informe del ararteko del año dos mil diecisiete sobre la infancia y adolescencia también

oportunidad de analizar en profundidad todos los grupos con representación en esta cámara y sin duda sacar iniciativas como esta

importantes de cara como se ha dicho aquí también a promover

también a salvaguardar sus intereses a escucharles y sobre todo también teniendo en cuenta que estamos ante un colectivo especialmente vulnerable también se ha señalado aquí el informe

que recoge en relación a la pobreza infantil y la realidad

relacionadas con la infancia y adolescencia para una especial protección de los menores cuando decíamos que es un colectivo especialmente vulnerable

que requieren un abordaje concreto como pueden ser situaciones de autismo situaciones de trastorno mental situaciones de trastornos de la conducta alimentaria

y las situaciones del maltrato que viven los menores y yo creo que también aquí hay que destacar los pasos también al hilo de las modificaciones que se han producido en la normativa estatal

en cuenta también las repercusiones que la violencia en el ámbito doméstico tiene

para los niños en este sentido nosotros al presentar nuestra enmienda a esta iniciativa

importante hacer una especial referencia a los niños y a los entornos donde se producen violencias en las que hay menores y en ese sentido sí tengo que agradecer a los grupos con los que he suscrito esta enmienda de transacción a la señora kortajarena y a la señora

haber sido sensibles a esa cuestión poco más que añadir también a parte de las referencias a las que hemos aludido en distintas intervenciones hasta el momento el informe del ararteko el informe de save de children sí me gustaría también que hay un compromiso

de este gobierno está un poco en duda a tenor de los últimos acontecimientos pero sí que esperemos que cumpla el calendario legislativo y que

son avances que estamos aprobando y llegando a acuerdos con iniciativas concretas se puedan incorporar también en la modificación de esta ley que como digo esperemos que esta vez y si no le tiraremos de las orejas al gobierno y estaremos ahí para

a esta cámara en los plazos comprometidos que es el primer cuatrimestre del dos mil diecinueve pues satisfacción y esperar también que el partido nacionalista vasco y el partido socialista
partidos del gobierno en la medida de lo posible pues también pueda suscribir un acuerdo que consideramos que es positivo y bueno y que supone un avance besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido

izateko la aplicación de la convención y lo dice expresamente el pacto vasco por las familias y la infancia implica necesariamente hacer de los niños y niñas titulares de derechos y no perceptores indirectos

en los que los menores a parecen como cargas familiares

experta y que ha investigado en torno a estos temas del interés superior del menor que es jorge que es un catedrático en derecho internacional dijo que esta es una visión muy interesante porque la convención de los derechos del niño que es del ochenta y nueve que tampoco es nada nuevo representa la consagración de un cambio de paradigma

sobre la consideración de los niños y las niñas por el derecho es un cambio de paradigma en toda regla los menores dejan

para convertirse en un sujeto titular de derechos que debe ser

yo creo que esto es un elemento que hay que señalar en la convención se considera que los menores tienen los mismos derechos que las demás personas los mismos pero lo interesante de lo que plantea esta convención es que está enfocada

tienen para garantizar que esos derechos que no son diferentes a los demás pero que son esos puedan ser ejercidos por las niñas y los niños y sean además

eta esaten du gainera que para la consecución de eso que se plantea de que los niños las niñas y los adolescentes

pues se dice que para esa consecución como eje central de ese cambio de paradigma que supone los planteado en la convención hay que incluir dos principios que son también derechos

que son el interés superior del niño y la niña y el principio que impone la obligación de escuchar los niños y niñas

y además se dice expresamente que los dos esos dos principios que son entendidos como derechos deben de leerse conjuntamente eso es lo que dice

que se establece como referencia nuestro pacto de familias con lo cual

yo creo que está muy claro que todo el mundo debería estar ya articulando las formas estableciendo las formas de establecer esos compromisos y esas garantías que establece la convención que tienen que asumir todas las personas todos los estados

muchas gracias presidenta señorías vamos a tratar en este punto

políticas sociales y actuaciones en la administración pública pero desde la presentación de esta proposición no de ley en julio del dos mil diecisiete ha pasado tiempo casi un año y desde entonces hasta la fecha también se ha avanzado mucho en esta materia

periodo de tiempo durante este periodo de tiempo se ha aprobado la estrategia vasca de inversión de las familias y la infancia en el que también han participado personas relacionadas con la administración

académico el segundo paso que se dio fue la aprobación teniendo en cuenta este documento de bases del pacto vasco de apoyo de las familias y la infancia suscrito en enero de este año por eudel diputaciones forales y gobierno vasco y que

amplio consenso y participación hemos debatido también recientemente un monográfico

donde se aprobaron numerosas resoluciones que se deberán de tener en cuenta junto

vasca de inversión en las familias y en la infancia en la aprobación en breve del cuarto plan de apoyo a las familias y a la infancia que

concretas y al que mi grupo parlamentario le daba especial importancia incluyendo la necesidad de aprobación del mismo dentro del acuerdo de gobierno firmado con el partido nacionalista vasco al principio de legislatura es por ello por lo que en nuestra enmienda a la totalidad cuando presentamos la enmienda a la totalidad el partido nacionalista vasco y el partido socialista en septiembre del año pasado hacíamos referencia a

vasca de inversión estos criterios esta consideración básica sobre los niños y las niñas

y a considerar dentro de la misma la inversión en la infancia como una inversión social y una herramienta

nosotros recogíamos eso en nuestra enmienda a la totalidad pero evidentemente

enmienda ya ha sido cumplida porque entre medias se ha aprobado ya la estrategia vasca de inversión para las familias y la infancia como he indicado anteriormente creo que todos los grupos parlamentarios de esta cámara estamos de acuerdo en que las políticas públicas han de

que se ha venido produciendo en los últimos años como consecuencia de la grave

medidas que vayan dirigidas a promover precisamente ese bienestar de la infancia y la adolescencia los estudios realizados las mayores dificultades económicas de las familias con hijos e hijas que han dado lugar al crecimiento de la pobreza infantil así como

para romper la transmisión intergeneracional de esas desigualdades y esto pone

y hoy se ha vuelto a poner de manifiesto por diferentes intervinientes en este pleno que también afecta de una forma

y a las compuestas por personas extranjeras es además un compromiso

en la convención del niño ya ratificada por españa en mil novecientos noventa y en la resolución del parlamento europeo de ocho de julio del noventa y dos

y además este principio de protección del interés superior se recoge dentro de la ley orgánica de quince de enero del noventa y seis de protección jurídica del menor

de atención y protección de la familia de la infancia y adolescencia de nuestra comunidad autónoma

legal de llevarlo a cabo a esa transversalidad se alude también en la propia estrategia vasca de inversión de las familias y la infancia

que está a punto de aprobarse y dentro del mismo

a esa transversalidad e incluso a la necesidad no solamente de incluirlo en este plan

de apoyo a las familias y a la infancia sino también se hacía referencia a la necesidad

de incluirlo en muchos planes estratégicos más hoy lo que hacemos es recoger ese compromiso político

de la enmienda transaccional que hoy han firmado

grupos el grupo proponente el grupo de elkarrekin podemos el grupo eh bildu y el partido popular nosotros vamos a pedir la votación por puntos porque evidentemente como estoy indicando

uno y el punto tres el punto uno porque es el que hace referencia

a la que me he referido a lo largo de mi exposición y que evidentemente

políticos de esta cámara compartimos como también compartimos el que íbamos a votar a favor de lo planteado en el punto tres en cuanto a incorporar el principio y medidas en el proyecto de ley sobre violencias machistas de manera que se aplique tanto cuanto se ejercen hacia niños y adolescentes como cuando

por parte de parejas o exparejas adultas hacia mujeres adultas y sus hijos e hijas menores de edad no hemos llegado a un acuerdo porque nos separaba solo el punto dos es decir qué departamento es el que tiene que encargarse de llevar a cabo estas

en la enmienda transaccional se hace referencia al departamento de gobernanza y autogobierno y nosotros consideramos que aunque sea una política trasversal no todas las políticas trasversales que son muchas

por el departamento de gobernanza y autogobierno para eso está también la coordinación que se realiza entre los distintos departamentos y la inclusión como he dicho

necesarios y que regulan materias interrelacionadas esta cuestión es por eso únicamente por lo que no hemos firmado esa enmienda transaccional pero como he indicado como estamos de acuerdo

en esa necesidad de trasversalidad que recoge el punto uno de la enmienda transaccional

dentro del proyecto de ley de violencias machistas que establece el punto tres nosotros votaremos mi grupo parlamentario va a votar a favor

en el punto dos simplemente porque no estamos de acuerdo con el departamento que se recoge que tenga que llevar esa actuación y

niños y niñas como sujetos de derecho e interés superior del menor de acuerdo a los establecido en la convención sobre los derechos del niño nire uste apalean

era quitar la mención que se hacía al departamento de gobernanza pues entendíamos que ese proceso debe ser liderado desde el área que está liderando en este momento esta cuestión

sin duda transversal en segundo lugar cambiábamos el plazo de seis meses a un año porque nos parecía más razonable a efectos prácticos

de las actuaciones a cometer en tercer lugar mantuvimos el

pero eliminando la referencia a hacerlo en colaboración con el ararteko ya que no veíamos al ararteko en posiciones ejecutivas máxime cuando a la postre a de evaluar y juzgar la actuación del gobierno también en esta materia

y en cuarto lugar en el segundo punto propusimos el priorizar el principio y las medidas a este respecto en el proyecto de ley sobre violencias machistas

una ya hablábamos en el primer punto de incorporar este principio en todas las políticas públicas

y dos es que desde un punto de vista jurídico de conformidad a lo dispuesto en el artículo once punto dos de la ley orgánica uno barra mil novecientos noventa y seis de quince de enero de protección jurídica del menor y en la redacción dada al mismo por la ley veintiséis barra dos mil quince

serán principios rectores de la actuación pública en relación con las personas menores de edad

por lo que en aplicación de la previsión anterior todas las administraciones públicas deben de incorporar el arriba citado principio en el diseño en la elaboración y en la planificación de las políticas públicas

a su ámbito de competencia con lo que entendíamos y va de suyo que se daría la incorporación del principio en el proyecto de ley sobre violencias machistas que se mencionaba y por ello mismo y en base a aquel niños y niñas como sujetos de derechos e interés superior del menor

parte de mi intervención en euskera como primer eje de trabajo en la actuación pública a llevar a cabo nos parecía más adecuado establecerlo como prioritario y de ahí la propuesta del verbo priorizar priorizar el principio del interés superior del menor y las consiguientes medidas en el proyecto de ley en este caso de violencia machista

o el impulso de la creación de mecanismos de participación infantil

afectan a más ámbitos que al de la violencia machista pero viendo que el acuerdo estaba cerrado

en lo que ya estaba acordado y en base a los matices que ya les he referido anteriormente y con absoluto deseo de acordar con absoluto deseo de acordar de la mano de ese nuevo tiempo que la señora kortajarena decía que mencioné hace varios debates

me alegro mucho del acuerdo señora guanche tómemelo con humor eh pero algunas veces

bueno si hay voluntad de acuerdo hasta la última hora es buena para alcanzarlo

y sí pediría tal y como ha mencionado la señora sánchez la posibilidad de votar por puntos el acuerdo que llegaron

tres grupos de elkarrekin podemos euskal herria bildu y partido popular votaríamos que sí al primer y al tercer punto de su transacción y

precisamente porque compartiendo la necesidad de la transversalidad no compartimos el empeño de que haya de hacerse desde el departamento de gobernanza

el mismo razonamiento habría que meter en el departamento de gobernanza tantas y tantas políticas que necesitan de ser transversales por lo demás

me alegro del acuerdo que hemos alcanzado y

seguiremos hablando porque tal y como creo que dijimos en el debate monográfico seguimos necesitando aclarar

eskerrik asko mahaiburu andrea la verdad es que no pensaba

la primera es que vuelvo a agradecer la voluntad y la disposición vuelvo a agradecer que hayamos llegado a este acuerdo porque creo firmemente que es un avance y me voy a quedar con eso

pero sí que creo que hay que matizar algunas cosas la primera en el monográfico dimos un paso hacia adelante por supuesto hoy damos otro que es sustancialmente mayor y que tiene que ver con el cumplimiento de una normativa que desde el año mil novecientos noventa tendría que estar en cumplimiento y no está

de que yo me quiera empeñar es una cuestión que emana directamente de la recomendación del ararteko y tiene que ver directamente con dejar de considerar

una política sectorial porque sectorialmente se considera sectorialmente se aplica

por el camino si este principio fuera de verdad transversal se lo he dicho a usted antes en privado señor urrutia y hoy lo repito para que lo oiga el conjunto de esta cámara si este principio fuera transversal no se habrían olvidado ustedes de incorporarlo por ejemplo a la proposición

de ingresos si este principio fuera transversal y tómemelo también usted con humor y con cariño

en las distintas diputaciones forales la renta de garantía de ingresos no se suspendería

con cuatro hijos tres de ellos con discapacidad reconocida las políticas de seguridad tendrían datos específicos sobre violencias sobre niñas y niños las políticas de transporte

permitirían que las niñas y los niños tuviesen voz propia las políticas de hacienda tendrían en cuenta también a las personas menores

como sujetos de participación política las políticas de salud

de sus madres o padres si miramos en detalle estoy segura que se me ocurrirían muchísimas más cosas pero como quiero acabar

voluntad me quedo con que hemos alcanzado un buen acuerdo y con que este acuerdo lo hemos alcanzado dando un paso sustancialmente mayor y mejor que el que dimos

tiene que ver con el respeto a los acuerdos que se podían llegar a alcanzar en este pleno monográfico yo me quedo de nuevo agradeciendo la generosidad

y la voluntad desde luego de los partidos que sustentan al gobierno señor urrutia señora sánchez por votar por puntos en positivo a los dos que van a votar y por abstenerse al que se van a

sino a que se aplique desde luego en todas las políticas y dependiendo del departamento de gobernanza besterik ez mila esker

batetik sánchez andreak esaten zuen que desde la aplicación del pacto y de la estrategia que está por venir y tal ha avanzado mucho en esta materia yo creo que eso está todavía por ver

cuando se traiga efectivamente ese plan al que usted hacía referencia y lo vamos a poder ver porque estamos planteando una visión transversal que supere

esta visión lo vamos a poder ver en las discusiones que tenemos encima de la mesa en los próximos meses

esta incorporación de manera transversal a la que se hacía referencia

ser escuchados y escuchadas se incorpora verdaderamente a todas las políticas y a esas decisiones que tienen que ver con todos esos elementos que ha citado muy bien la señora guanche pero que tienen que ver con cosas muy grandes del día a día y tienen que ver con cosas mucho más pequeñitas

después de un proceso participativo se toma la decisión de poner un parque de juegos en una plaza los vecinos se quejan y las vecinas se quejan porque hay mucho ruido y se decide quitar ese parque pues esa decisión tiene un efecto en la vida de esos niños y niñas que viven en ese barrio y desde luego en su derecho de jugar y de ser feliz que es brutal y en ese tipo de decisiones todavía no está presente y no está presente también en otras medidas

que luego tuvieron que ser corregidas por ejemplo en gipuzkoa porque tenían un efecto brutal en las familias que tenían

muy importante y por eso el acuerdo que adoptamos hoy es muy importante es muy importante eta hemen esaten zigun urrutia jaunak

el tema de priorizar y no incorporar nos hacía referencia a una normativa no he cogido nota de cuál era esa normativa y en la que ya se hacía referencia a que esto era de obligada aplicación

aplicación este gobierno no aplica el interés superior del menor

todo el rango de políticas públicas beraz nik uste positiboa dela

sí desde el escaño yo en mi intervención he indicado que precisamente ha pasado

proposición no de ley y lógicamente en este periodo de tiempo ha dado tiempo a que pueda aprobarse afortunadamente la estrategia

se ha aprobado el pacto estamos pendientes de que venga próximamente este cuarto plan para las familias en infancia que todos le damos una extrema importancia

pero que también dentro de esa estrategia se recogía esa necesidad de transversalidad porque lo marca la propia norma y además

para proteger los derechos de los niños y de las niñas

dentro de mi intervención y evidentemente

en que se incluya en ese proyecto de ley de violencia machistas que está por venir todo lo referente a esta materia solo no estábamos de acuerdo

a ser llevadas desde gobernanza entonces

y realización de unas políticas coordinadas también es muy importante y por eso considerábamos que no estábamos de acuerdo en ese punto dos y por eso hemos pedido por puntos que agradecemos que haya sido aceptada porque nos permite evidentemente como estamos de acuerdo con el punto uno y tres votar

por lo que hemos indicado por lo del departamento porque en el resto de la filosofía yo creo que estamos todos los grupos de esta cámara lo hemos manifestado en nuestras intervenciones

de acuerdo y por parte de mi grupo desde luego le damos extrema importancia a toda esta cuestión y lo procuramos tener en cuenta

y en todos los acuerdos que nosotros llevamos a cabo como también lo hemos tenido en cuenta en la proposición de ley

para intentar evitar esas desigualdades que sufren las familias con hijos e hijas mayores complementos para que puedan ser beneficiados en ese sentido yo creo que sí se tiene en cuenta que se han cambiado

proposición de ley que evidentemente tendremos que debatir e iniciar su proceso

su recorrido sin más pues bueno yo agradecer que se pueda

porque todos estamos de acuerdo en el fondo solo nos separa una diferencia de

fíjese señora guanche yo no tenía ganas de salir y no he salido pero bueno sí que

algún matiz les voy a hacer simplemente para decirle esaten zuen kortajarena andreak

que es una cuestión que más o menos tenemos todos claro el problema que tenemos sobre salud y seguridad en el trabajo y es verdad pero creo que en parte porque lamentablemente y creo que va usted a compartir conmigo que después de escuchar al representante de confebask en la comisión a la que usted ha hecho referencia pues yo no tengo

claro pero es verdad que en esta cámara o al menos de lo que escuchamos en la comisión yo creo que sí se reconoce de manera generalizada y hoy lo escucharemos desde luego sí es la posición de mi grupo

tenemos un problema de seguridad y salud en el trabajo en euskadi seguramente también en otros territorios seguramente no también lo tienen pero que tenemos un problema y un problema grave y

tenido en la comisión de los sindicatos de diferentes agentes sociales y también de lo que se deduce de las propias palabras del representante de confebask

cuando estuvo aquí yo creo que más allá del debate que había en origen de esas comparecencias

lo que ya hemos hablado el repunte de accidentes si las razones es la crisis o son otras lo que creo que ha quedado

responde a dos elementos muy claros uno es la precariedad que se ha instalado de manera potente en nuestro mercado de trabajo una cuestión sobre la que también hemos venido debatiendo en diferentes plenos con diferentes iniciativas y un segundo que yo creo que sería un poco la novedad hoy

que es el incumplimiento generalizado de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de nuestras empresas

por la comisión y esta es la razón por la que a nuestro grupo

iniciativas que vayan o que busquen el refuerzo de la inspección de trabajo

de las herramientas principales que tenemos desde la administración pública precisamente

que se cumplan las obligaciones que tienen las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo que como digo hoy en día de manera generalizada hay un incumplimiento

de las diferentes comparecencias que hemos podido escuchar las y los parlamentarios de la comisión de trabajo y justicia por lo tanto yo creo que el debate más allá

inspectores o subinspectores que necesitamos yo creo que el debate es general inspección de trabajo en estos momentos en euskadi está muy lejos de poder

y eso lo sabe cualquier sindicalista digo sindicalista porque normalmente los sindicalistas ponen continuamente denuncias en la inspección de trabajo un trabajador igual

seis o siete años después no pone una denuncia pero los sindicalistas saben muy bien porque ponen continuas denuncias que inspección de trabajo no llega

de falta de profesionalidad de los inspectores y de las inspectoras de trabajo sino que es una cuestión de carga de trabajo que no pueden asumir y cualquiera que vea la mesa de trabajo de una inspectora o inspector de trabajo gloria seguro que esto lo conoce muy bien

con un montón de expedientes un montón de hojas un montón de carpetas y eso repercute

no sea en estos momentos eficiente y esto no es criticar la labor de los inspectores sino criticar que en este momento la herramienta que tiene que encargarse de eso no abarca ni de lejos los problemas

la iniciativa nosotros hicimos una enmienda con algunos planteamientos que creíamos que inciden

una manera mayoritaria en la transacción a la que se ha llegado a un acuerdo que los voy a describir

hay que aumentar los medios materiales y humanos de la inspección de trabajo creo que aquí ha habido un gran consenso en este sentido lo planteaban los diferentes

elemento que es incidir en el control exhaustivo de eso de lo que muchas veces nos hablan ustedes y que es verdad que nos dicen los sindicatos que es la prevención

exhaustivo en los planes de evaluación eso nos parece fundamental una de las cosas que hemos visto también en las comparecencias

o no se hacen o no se hacen correctamente o luego no se aplican y por lo tanto nos parece que es un buen mensaje que nosotros le digamos al gobierno y a inspección de trabajo

de esos planes de evaluación que seguramente discutiremos pero yo sostengo que en este momento no hay un control exhaustivo no lo hay porque como digo no hay

no se hace y luego el tercer elemento que nosotros planteábamos era el que tiene que ver

y por qué planteábamos esto porque si nos parece grave que haya un incumplimiento generalizado de obligaciones que además son obligaciones legales

salud y seguridad en el trabajo en cualquier empresa nos parece absolutamente inaceptable que empresas que de una u otra manera obtienen sus recursos sus beneficios

una materia tan delicada como la seguridad y la salud en el trabajo y todas y todos conocemos ejemplos de sobra de que esto pasa y la mayoría de los ejemplos que conocemos

cuando han muerto dos trabajadores de una subcontrata que trabajaban para una empresa que hacían no sé qué obras para la administración y por lo tanto nos parece que hay que hacer especial en esa cuestión el elemento que nos ha recogido de lo que nosotros proponíamos es el que tiene que ver con las medidas disuasorias

yo no sé si porque no se comparte o exactamente por qué porque

lógicamente pero nosotros pensamos que precisamente hay que incidir en esto porque precisamente de lo que pudimos escuchar al representante de la patronal nosotros

pero lamentablemente las medidas disuasorias y las sanciones hoy en día tienen que ser parte de la política preventiva porque muchas y muchos empresarios lamentablemente solo atienden a la política preventiva

un coste mayor y lo deducimos de la comparecencia que tuvo representante de confebask una intervención bochornosa en la que yo creo que sintieron vergüenza todos los representantes de los diferentes grupos que estábamos en la cámara

las y los parlamentarios de todos los grupos no desde luego solo de mi grupo

vino a intentar quitar hierro al problema de seguridad y salud en el trabajo vino a discutir

vino a decir más o menos que era una invención de los sindicatos cuando las encuestas y las estadísticas oficiales no las hacen los sindicatos lo cual nos parece unas acusaciones graves y llegó a decir que efectivamente lo que se estaba dirimiendo sobre lo que se consideran accidentes o no accidentes de trabajo es al final quién paga y ahí puso el acento y por lo tanto para nosotros es un indicativo más que

desgraciadamente las medidas disuasorias y las medidas que tienen que ver con las sanciones hoy en día desde nuestro punto de vista no se pueden separar de lo que es la prevención en materia de salud y seguridad en el trabajo

cuando habla de sanciones y cuando habla de medidas disuasorias y medidas económicas disuasorias no está hablando solo desde un punto de vista de castigo

las empresas aplican mucho más la prevención si valoran que eso les va a salir más caro en términos económicos ojalá lo valorasen también en otros términos pero eso es una realidad que a nosotros nos parece que hoy en día no se puede negar bueno nosotros estamos

se ha llegado ahora sí nos parece que esta transacción creo que esto es importante obliga o va a obligar o debería obligar a que se dediquen más recursos económicos al departamento de trabajo y justicia que nosotros ya lo hemos dicho también y lo dijimos cuando se presentaron los presupuestos de la comunidad nos parece que este departamento está infrafinanciado y además dentro del departamento de trabajo y justicia nosotros ya saben que no compartimos

también tiene una falta de recursos importantes nada más eskerrik asko hernández jauna

gracias señora presidenta buenos días a todos efectivamente tal y como

y se ha comentado aquí por la portavoz que ha presentado la misma en los últimos meses

en torno a la siniestralidad laboral a sus posibles causas y a las medidas que en su caso puedan adoptarse para limitar la misma o para eliminar la misma es más no hace mucho tiempo en noviembre del año pasado estuvimos también

una moción también del grupo eh bildu relativa a este mismo asunto y como dije en ese momento y creo que es bueno

los sindicatos cuando dijeron cuál es la filosofía con la que tenemos que afrontar este asunto

asociar trabajo y accidente laboral como algo que es inevitable y que en ese sentido las administraciones públicas debemos tomar las medidas que estén a su alcance para ello se hicieron numerosos planteamientos como se ha dicho aquí sobre las causas y sobre las fórmulas para acabar con la misma

de las causas y que ya debatimos también en noviembre del año pasado es la precariedad laboral y luego se abordó también se ha abordado por parte de los distintos representantes que han comparecido pero sobre todo de los

los medios personales y materiales de la inspección de trabajo en virtud como se ha dicho también aquí en virtud de un decreto en el año dos mil once hay una serie de funciones que son traspasadas a euskadi y en este momento por lo tanto tenemos en euskadi dos administraciones distintas encargadas de la inspección por una parte la seguridad social y la lucha contra la economía

de riesgos laborales y relaciones laborales y empleo son competencia del gobierno vasco las dos inspecciones trabajan conjuntamente en el país vasco la estatal y la autonómica coordinan la planificación de sus actuaciones estructurándolas en

economía irregular prevención de riesgos laborales y relaciones laborales y empleo

poner todos los medios a nuestro alcance para hacer más sí pero

que no es ni se ajusta a la realidad ni es justo tampoco decirlo así

la inspección de trabajo y seguridad social detectó e hizo regularizar

y recaudó treinta coma cuatro millónes de euros para la seguridad social también por territorios históricos

y cuatro coma seis millónes en gipuzkoa lo que equivale al pago anual

pensiones de jubilación como resultado de esas actuaciones la inspección de trabajo impuso dos mil diecisiete sanciones por importe de casi tres millónes de euros

social como le decía es importante reforzar la plantilla y reforzar los medios materiales

sí pero que se hacen cosas y que se están haciendo cosas es justo decir que también en primer lugar

decía la propia iniciativa y dice la enmienda de transacción a la que se ha llegado aumentar el número de inspectores y de subinspectores que se cubran las plazas ya creadas

que ello se haga así también hemos de poner de manifiesto la ley veintitrés barra dos mil quince ordenadora del sistema de inspección de trabajo y de seguridad social crea una nueva escala de seguridad y salud laboral con el cuerpo de subinspectores laborales

consolidando y reforzando el papel de la inspección de trabajo en este ámbito para seguir avanzando en la reducción de la siniestralidad laboral y de la mejora en las condiciones de trabajo el tres de este mismo mes de mayo se ha incorporado a la inspección de trabajo la primera promoción de subinspectores de seguridad y salud laboral con treinta y dos

con relación a lo relativo a la inspección de trabajo la regulación de la normativa también se está produciendo una modificación a nivel nacional mediante real decreto ciento noventa y dos barra dos mil dieciocho de seis de abril se procede a la aprobación

regulándose la estructura central la estructura periférica los órganos de dirección y de participación institucional y lo relativo al régimen económico patrimonial y de contratación pero como décimos hay que señalar y destacar lo decía yo al principio

a seguridad y salud en el trabajo las funciones corresponden a los inspectores de trabajo dependientes de nuestra administración no cabía por tanto lo que se establecía en la iniciativa original y yo también lo hablaba con la señora sánchez que se reclame la competencia total en el este ámbito porque en ese ámbito ya lo tenemos

o no de la obligación de contribución al sistema de la seguridad social en este aspecto hay que señalar que el tribunal constitucional tiene declarado que la potestad sancionadora y por lo tanto también la función inspectora

o que recaigan sobre datos instrumentales referidos al nacimiento y mantenimiento de la obligación de contribuir al sistema está reservado como digo según el tribunal constitucional al estado por eso nosotros no hemos firmado la enmienda de transacción porque no estábamos de acuerdo con ese segundo punto

vamos a votar de manera favorable porque como se ha dicho aquí

se ha llegado finalmente la enmienda de transacción este grupo está de acuerdo

no solamente ahora se va a llegar a un acuerdo ya se habló ya

la administración es decir el control de las empresas que trabajen para la administración pública para vigilar el cumplimiento estricto de la legislación en materia

en este aspecto cuál es la calidad en el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales y del cumplimiento de la normativa por parte de las empresas contratadas

señalar y se señaló en noviembre y lo quiero volver a poner de manifiesto aquí

públicas en euskadi pero en cualquier caso como siempre hay margen de mejora pues es importante seguir trabajando manteniendo las medidas implementándolas con otras nuevas para que

cumplan estrictamente la normativa y tengan asumida esa cultura de prevención porque nosotros creemos que las instituciones públicas además de vigilar el cumplimiento de las normativas tienen que dar también ejemplo y tienen que ser las primeras que obligan a ese cumplimiento

por ello estamos de acuerdo con el punto tercero y como he dicho lo votaremos

un punto relativo a seguir efectuando un control exhaustivo de las evaluaciones de riesgo y de las planificaciones preventivas

yo creo que la prevención es la mejor manera de evitar los accidentes vigilar

es la mejor manera de evitar esos accidentes laborales

es que los mismos sectores en los que se producían los siniestros hace diez años hace más de una década son los mismos en los que se producen ahora los incumplimientos

por lo tanto nosotros creemos que se debe vigilar esos planes se debe establecer una serie de calendarios para el cumplimiento de esos planes

fundamental porque hay un hecho insoslayable que es la repetición ad eternum

lo que hay que hacer es analizarlo e intentar poner todas las medidas en lo que a nosotros nos concierne por parte de la administración pero también por parte de las empresas

para que el cumplimiento efectivo de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales

sí gracias presidenta ya debatimos

colateral en esta materia en el pleno del dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete con la moción consecuencia de interpelación donde podemos

llegar a acuerdos en materia de siniestralidad para mi grupo los socialistas vascos nos parece fundamental la actuación del control de la inspección de trabajo en aras a velar por el cumplimiento de la normativa

y la importante labor que muchas veces se nos olvida de asesoramiento que realizan en las áreas de trabajo prevención de riesgos laborales empleo y seguridad social todo este colectivo que consigue evitar

muchas situaciones pero que no se pueden cuantificar porque simplemente al final se han conseguido

y por ello el departamento de trabajo y justicia está trabajando de continuo en el fortalecimiento de la inspección de trabajo dotándole

y materiales para poder llevar a cabo esta labor inspectora con la mayor efectividad posible y tiene previsto seguir haciéndolo en el futuro ya señalé en aquella intervención de noviembre del año pasado que había que destacar que la inspección de trabajo durante el año dos mil diecisiete

sus actuaciones en campañas de control de contratos a tiempo parcial y temporales dirigidas a reducir la precariedad laboral que tanta incidencia puede en la siniestralidad laboral y durante el año dos mil dieciocho continúa realizándolo indicaba que en este momento en aquel momento los recursos con los que se contaba en la inspección de trabajo del gobierno

y la subdirectora de la inspección se había producido un refuerzo

inspectores en la plantilla y luego se cubrió una plaza a

de la ope con lo cual en la actualidad contamos con treinta y ocho inspectores en la plantilla en los tres territorios históricos y

salud laboral bueno este cuerpo de subinspectores está ahora produciéndose todo el despliegue territorial porque están recientemente

en esta petición de las plazas que se habían solicitado solo

para el concurso de septiembre de este año en un principio tres plazas y vendrán ya con posterioridad en otros concursos

las otras tres que quedan pendientes porque evidentemente cuentan todavía con pocos efectivos y tienen que producir o llevar a cabo el despliegue

en todo españa este cuerpo de subinspectores

se creó a nivel nacional dentro de la ley veintitrés del dos mil quince y viene a reforzar las actuaciones que dentro del ámbito de la inspección se pueden llevar a cabo y efectuar en materia de seguridad y salud laboral y que cambia la situación anterior porque los

y de seguridad social no tienen competencia para actuar en materia de seguridad y salud laboral este nuevo cuerpo sí

vendrán a reforzar en estas materias todos lo actuado por la

por el resto de inspectores de trabajo y seguridad social de la plantilla no podemos olvidar sin embargo

de trabajo no transferidos pertenecientes a la administración general del estado porque todavía no se ha llevado a cabo la transferencia en materia

de seguridad social contamos por tanto con treinta y ocho transferidos y veintiséis no transferidos con lo cual en nuestra comunidad autónoma

que mantienen la unidad de acción que eso no lo podemos olvidar es decir que con independencia de quién inicie la actuación

dentro de la comunidad autónoma en sus actuaciones pueden efectuar todas las competencias que sean necesarias en las cuatros áreas fundamentales tanto

salud laboral con lo cual todos pueden actuar en materia de seguridad y salud laboral

por lo que el fortalecimiento de la inspección de trabajo realizando en los últimos años y se va a seguir trabajando en ello también se ha trabajado en el área de la formación permanente llegando a un acuerdo con la escuela de

a nivel nacional de tal forma que los inspectores transferidos pueden participar también en todos los cursos de formación ya sean

organicen por la escuela de formación de la inspección de trabajo a nivel estatal como los inspectores de la administración general del estado también pueden participar

se organizan dentro de nuestra comunidad autónoma con lo cual se consigue una mayor calidad también en la formación que se imparte a todos los inspectores de trabajo

sin embargo no podemos olvidar que se van a llevar a cabo importantes cambios a nivel nacional se tiene que producir un cambio dentro de la ley ordenadora de la inspección de trabajo la ley veintitrés barra dos mil quince de veintiuno

porque dentro de la misma se crea el organismo autónomo de la inspección de trabajo y eso cambia la situación que existe en la actualidad que ahora

era una dirección general la de la inspección de trabajo y eso va a obligar

a realizar una modificación de la relación de puestos de trabajo a nivel nacional habrá que esperar no obstante

contar con presupuestos para que se pueda empezar a llevar a cabo porque evidentemente tendrá que entrar para los presupuestos del año dos mil diecinueve porque aunque el organismo autónomo está creado a nivel nacional

con lo cual tardará todavía en arrancar ese cambio a nivel nacional y también se va a producir de rebote un cambio en la ley de infracciones y sanciones en el orden social y en el reglamento de procedimiento sancionador para adaptarlo a estas modificaciones de la ley veintitrés barra dos mil quince y también a la de la ley de procedimiento administrativo de

por tanto se va a tener que elaborar una nueva

una modificación una revisión en la colaboración con las comunidades autónomas y los convenios firmados con las comunidades autónomas en las que se ha producido la transferencia de la inspección de trabajo para adaptarlo también a este nuevo organismo autónomo que se crea

por tanto nosotros creemos que la enmienda transaccional que hemos firmado es buena porque va en esta línea seguir reforzando y seguir trabajando por el fortalecimiento de la inspección de trabajo

en el área de inspectores de trabajo como en los subinspectores de seguridad y salud laboral pero también en seguir trabajando

que no han sido todavía traspasadas o pasadas al gobierno vasco como es en el ámbito del régimen económico de la seguridad social pero no solo pedimos las transferencias si bien en esas transferencias lo que se está pidiendo dentro

transfieran también los recursos humanos el número de inspectores también necesarios y podamos tener la totalidad de los mismos

un poco por qué se ha metido una serie de cuestiones y otras

haciendo voy a explicarlo con más profundidad en mi segunda intervención

más relevantes aunque también se vengan efectuando actuaciones en este sentido como son

de la legislación en materia de seguridad social por parte de las empresas que trabajan en las administraciones públicas y por parte de elkarrekin podemos

referente a seguir trabajando y realizando actuaciones

de riesgos porque tenía especial importancia y nosotros

defendimos que si se metía o se hacía referencia a estas evaluaciones de riesgos también considerábamos que era importante vincularlo con la planificación preventiva porque una evaluación de riesgos sin una vinculación con una planificación preventiva pues

de dónde están esos riesgos pero no les estás poniendo un calendario no les
estás poniendo una planificación amaitzen joan sánchez anderea que tengas que exigir y que tengas cumplir

si se metía la evaluación de riesgos la referencia también a la planificación preventiva porque nos parecía

mucho más completa porque es el estudio del riesgo más el calendario de exigencia del cumplimiento a través de esa planificación preventiva de esos riesgos eso se viene haciendo yo creo que también es importante evidentemente que se siga haciendo hincapié en esa materia por eso

se podía incluir para tenerlo en cuenta dentro de la enmienda

legedia betetzeko y esto que acabo de decir tiene su reflejo en los compromisos asumidos por el gobierno vasco

dentro del eje un crecimiento sólido y con más y mejor empleo un compromiso de lucha contra el fraude laboral y la inspección de trabajo elementos fundamentales

contenido real al compromiso de más y mejor empleo para ello se contemplan una serie de iniciativas

una cuestión que como vemos coincide claramente con el objetivo de la proposición no de ley que a propuesta de euskal herria bildu estamos debatiendo hoy aquí

es necesario trabajar en todos los ámbitos y entre todas las partes implicadas empresas sindicatos las y los trabajadores y también es necesaria la participación de la administración

lleva tiempo trabajando en esta línea con el objetivo de garantizar que se den los niveles de seguridad y salud que sean precisos para lo que utiliza las herramientas que están en su mano

el compromiso del gobierno con la prevención de los riesgos laborales ha sido desde siempre evidente kontu honetan ez gara hasiberriak azken urteotan

en ocasiones cuando oímos determinadas afirmaciones en esta cámara

y desde luego nuestro grupo creemos que esto no es así y concretamente en este tema me congratula también haber visto hoy como desde otros grupos también se reconoce

avances se han dado pases en materia de salud y seguridad en el trabajo aún así

obviar la realidad una realidad que evidencia que no se cumple la normativa en prevención de riesgos laborales como se debiera y por tanto queda camino por recorrer hay que seguir incidiendo y trabajando desde diferentes ámbitos como

una verdadera cultura de la prevención eta eusko jaurlaritzaren

para el gobierno desde luego también esta es una cuestión básica en la cultura de la prevención la adquisicion de hábitos de seguridad que estos hábitos de seguridad se

este es el camino es uno de los caminos hay otros ámbitos también desde los que el gobierno actúa en su firme compromiso con la salud y seguridad en el trabajo y uno de ellos y fundamental es el de la inspección de trabajo eta halaxe dago gobernu programan jasota esan bezala qué duda cabe que la inspección de trabajo juega un papel muy relevante para velar por el cumplimiento de la ley en materia laboral prevenir situaciones no deseadas y en su caso

línea reconociendo que se han hecho mejoras es cierto que como he dicho hace un momento hay camino por recorrer hay bastante camino por recorrer y por ello nos parece que es un paso muy importante en esta apuesta por la prevención de riesgos laborales

de la inspección en este objetivo básico de vigilar el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y salud laborales por parte de todos los actores

de ahí la necesidad de disponer de medios suficientes y adecuados de contar con estructuras eficaces de prevención de control de asesoramiento que coadyuven de forma eficaz

para dar cumplimiento de la manera más eficiente posible al ejercicio de la función inspectora que compete

a la reducción de los riesgos laborales a la investigación de los posibles accidentes laborales entre otras

fundamentalmente para que realmente se garantice a las personas trabajadoras

a que lo hagan con unas condiciones que garanticen un entorno de trabajo seguro y saludable sin ninguna duda y en esta línea está el gobierno

cómo está organizado el sistema de inspección cómo se funciona cómo se trabaja

de restructuración de modificaciones que probablemente implicará que se tengan que hacer adaptaciones nos ha dado la señora sánchez detalles muy concretos y efectivos de personas

pero creo que sí es importante volver a remarcar el esfuerzo en el refuerzo que se viene haciendo en el ámbito de la inspección

y en este sentido la enmienda que hemos transaccionado la mayoría de los grupos de la cámara

reforzando la inspección de seguridad y salud en el trabajo e instando también al gobierno central al gobierno español a que se incluya en la transferencia de la gestión económica de la seguridad social la totalidad de las inspección de trabajo para completar

en aras a una gestión íntegra y por tanto más eficaz de la misma

en materia de seguridad y salud en el trabajo enmienda de transacción que además como nos ha adelantado el grupo popular la señora llanos

van a apoyar yo ya voy a terminar agradeciendo a todos los grupos la predisposición

consensuar un texto que nos ha permitido llegar a este acuerdo encaminado a que se continúe con el refuerzo e impulso de la inspección de trabajo desde la que se

salgo básicamente para negar mi catastrofismo yo no sé

a cualquier cosa le llaman ustedes catastrofista vamos a ver yo no he dicho en ningún momento como usted ha dicho que yo he dicho que no se ha hecho nada

muy al contrario lo que yo he dicho y además reconozco hoy que en cuanto

he encontrado un mayor punto de autocrítica por parte de los grupos que apoyan al gobierno que en otros debates que hemos tenido sobre el tema de la precariedad entonces yo lo que he dicho fundamentalmente que tenemos un problema grave de seguridad y salud en el trabajo que lo tenemos que existe que algunos lo niegan fundamentalmente confebask cuando vino a comparecer

cada uno con sus expresiones y con sus matices y a mí esto me parece bueno porque creo que negar los problemas es malo

identificar cuáles son los problemas para resolverlos y para mi grupo desde luego este es un problema

ese problema que tiene un determinado tamaño que se produce por la precariedad en los empleos y

porque se incumple la normativa legal

más o menos extendida y generalizada es un problema de un tamaño que el tamaño que tenemos de inspección de trabajo

en estos momentos es incapaz de abordar eso no quiere decir que no se hagan cosas que no se haga ni tan siquiera vengo a decir que no se haga en la buena dirección hoy no he venido ni tan siquiera a decir esto

así tenemos una herramienta así y por lo tanto a nosotros nos parece

es que efectivamente tenemos ese problema y que tenemos que tener una inspección de trabajo que pueda abarcar este problema en cuanto a las cuestiones que se introducen y no se introducen yo lamento que a gloria no le haya dado tiempo

expresarle mi opinión pero yo creo que usted me va a decir o de alguna manera ya lo ha apuntado que lo que no se introduce de lo que nosotros decíamos es porque ya se está haciendo hombre yo creo que

ustedes consideran que ya se está haciendo de manera insuficiente y así lo han expresado por lo tanto no vemos la razón para que unos elementos que nosotros proponíamos se hayan incluido y otro

no se haya incluido no sé si hay un especial miedo a hablar de sanciones que yo creo que teníamos que hablar de ello de manera natural porque creo que es parte de la política preventiva también

en estos momentos por lo tanto mi grupo se queda con que la transacción es buena y con que el mensaje de que tenemos

y salud en el trabajo producida por la precariedad y que de manera más o menos generalizada hay un incumplimiento de la normativa en cuanto a seguridad y salud en el trabajo

reconocemos todos los grupos de esta cámara y a mí esto me parece bastante importante eskerrik asko hernández jauna euskal talde popularraren ordezkaria

presidenta desde el escaño porque simplemente para hacer dos puntualizaciones una es cierto que en este momento existe yo lo he dicho dos administraciones y dos inspecciones que actúan sobre materias y sobre campos de inspección diferentes pero están lo he dicho también están coordinadas

no existe una disfunción a la hora de ejercitar la inspección como digo cada una en los ámbitos que le correspondan y señor hernández

igual el término catastrofista es excesivamente drástico pero también he de decirle que yo creo que también usted es excesivamente drástico cuando dice

generalizado por parte de las empresas en la normativa de prevención de riesgos laborales yo creo que no hay un incumplimiento generalizado que hay incumplimientos que hay muchos desde luego

usted ha dicho en la anterior intervención que la labor que tienen que llevar a cabo los inspectores supera con mucho y de largo

creo y creo que eso además lo hemos reconocido todos que es necesario dotar de más medios personales y materiales a la inspección

creo desde mi punto de vista que es excesivamente drástico que se puede mejorar desde luego que hay un problema desde luego pero yo se lo he dicho

que la filosofía con la que hay que enfrentarse a este asunto es con la filosofía que algún sindicato estableció aquí y que yo creo que salió más

debate que tuvimos en noviembre con que la existencia de un solo accidente laboral y no le digo ya si ese accidente es mortal es suficiente porque para la familia

para la persona la familia de esa persona fallecida desde luego le da igual

el suyo es el que le importa y ese es el que tenemos que hacer todos para evitar nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

bueno en primer lugar desde luego como no podía ser de

a hacerlo en la primera intervención es agradecer el enorme esfuerzo que

en este punto en concreto hemos hecho todos los grupos de esta cámara creo que hemos estado hablando largo y tendido hasta que hemos conseguido el acuerdo que hemos firmado la enmienda transaccional que hemos firmado hoy entre el del grupo nacionalista vasco el grupo socialista el grupo eh bildu y elkarrekin

es importante recoge cuestiones muy importante para trabajar todos en lo que estamos de acuerdo bueno seguir fortaleciendo la inspección de trabajo y en nuestras exposiciones todos creo que estamos de acuerdo en que ha habido importantes avances yo creo que eso no lo hemos negado ninguno de los grupos intervinientes lo que yo no puedo estar de acuerdo es en la manifestación de que tenemos un problema grave hombre problema

problema va a haber siempre incumplimientos tenga sesenta y ocho o tengas quinientos no vas a poderlos evitar nunca algún incumplimiento va a haber pero desde luego estamos mucho mejor que en otras épocas yo he estado en inspecciones en las que éramos dos y tres personas para toda la provincia donde ahora hay doce o veinte personas evidentemente no podemos estar diciendo que ahora tenemos

infinitamente mejor a otras etapas en las que los efectivos han sido muchísimo más bajos y estamos hablando que tenemos ahora mismo

que junto con los no transferidos están actuando sesenta y tres inspectores es que nunca en la historia hemos tenido tantos inspectores actuando en nuestra comunidad autónoma por tanto no podemos hablar de que ahora tengamos un problema grave de seguridad y salud en ese sentido porque estamos muchísimo mejor en efectivos que hemos estado en otras épocas de acuerdo que todos los que tengamos más siempre será mejor cuantos más tengamos pues más actuaciones se podrán efectuar

yo llevo treinta años de historia conocidos con las que se han vivido en otros momentos es que

efectivos eso no quita para que evidentemente se tenga que seguir trabajando por tener más yo estoy de acuerdo con ello y por eso he firmado esta enmienda transaccional porque todo lo que hagamos

lo he explicado en mi intervención cómo se ha ido incrementando la plantilla también

incorporación de esa plaza que quedó vacante para

seguir incrementando la plantilla se han pedido del nuevo cuerpo de subinspectores de seguridad y salud laboral

para seguir luchando en materia de prevención de riesgos laborales y muy someramente porque como dice el señor hernández pues ahora

nosotros dijimos de no querer de no meter alguno de los puntos que planteaban en su enmienda a la totalidad porque era como

miedo a las multas económicas todo lo contrario ahora hay muchos más inspectores como he dicho con más inspectores se ponen muchas más multas que hacen más tiempo porque son más efectivos efectuando

sancionadora pero es que se vienen haciendo entonces ponerlo otra vez nos parecía reiterativo y yo creo que nada más lejos de la realidad el que nosotros nos de miedo todas las multas económicas yo siempre he defendido y lo he dicho aquí en esta tribuna que desgraciadamente por el miedo al palo

poner esa actuación esa multa o esa actuación sancionadora pues en muchas ocasiones

y luego atender las recomendaciones sindicales que lo recogían en algunos de esos puntos pues viene haciendo habitualmente siempre

comité de empresa o los delegados de prevención con lo cual en ese sentido

una mayor relevancia y en lo que no estábamos de acuerdo es que se pueda retirar cualquier ayuda económica ante cualquier incumplimiento en materia de seguridad y salud laboral que también estaba recogido en alguno

y en la normativa existente en las empresas que

laboral existe una imposibilidad de poder contratar con ellas a nivel de la administración

pero llevar eso a cualquier tipo de infracción en materia de seguridad social que se haya podido cometer se quedan sin ningún tipo de ayudas las empresas que hayan podido

cometer una infracción no nos parece ajustado o proporcionado

de impedimentos en determinados casos graves y que desde luego la administración tiene que cumplir pero no nos parecía que se tuviera

a todo tipo de incumplimientos el perder todo tipo de ayudas de cualquier tipo porque ahí no se establecía ningún tipo de limitación en ese sentido
y bueno como he dicho las que sí hemos visto que eran amaitzen joan relevantes de tener en cuenta las hemos metido y agradecer el acuerdo alcanzado nada más eskerrik asko sánchez anderea

yo muy brevemente le decía a la señora sánchez que le cedía mis cinco minutos si quería porque yo

un par de cositas reconocer los problemas no es catastrófico desde luego que no señor hernández estamos de acuerdo lo que pasa en que en ocasiones la manera en que se explican o se exponen sus problemas pueden dar lugar a esta sensación de catástrofe sin más por puntualizar es cierto que hoy hemos tenido

estamos todos muy encaminados realmente a avanzar e intentar conseguir que todos estos servicios que realmente

que van a intentar y conseguir bueno intentar conseguir que el ámbito de la siniestralidad

que es verdad que el hecho de que exista un accidente laboral

hoy se ha dicho y se ha dicho yo creo que en todas las ocasiones en que hemos tenido la oportunidad de hablar de esta cuestión también se ha comentado lo mismo es mucho siempre se ha reconocido así y lo hemos reconocido todos los grupos

ahí estamos de acuerdo yo creo que nunca hemos dejado lugar a duda nuestro grupo nunca ha dejado lugar a duda a la necesidad de seguir

el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo en lograr que todas las personas trabajadoras en su entorno laboral tengan un entorno seguro y saludable no hay ninguna duda y creo que en esto como estoy diciendo estamos coincidiendo hemos coincidido todos los grupos el acuerdo de hoy es positivo y yo me voy a quedar con esa parte voy a quedarme con lo positivo

de eso se trata de que seamos capaces entre todos los grupos de llegar a consensuar y acordar cuestiones

el uno tres y cuatro en un grupo y el dos aparte arazorik ez ezta bozketa puntuka

en el día internacional contra la lgtbiq fobia

gays transexuales bisexuales intersexuales que todavía hoy y también aquí en euskadi siguen sufriendo diferentes tipos de violencias

y amar y también recordar la necesidad de que todas

y lo queremos para todas para las personas que nacimos en euskadi y para las personas que llegan a euskadi

orientación sexual o de identidad de género que se ven obligadas a huir de sus casas y de sus países

y nos conecta de forma directa con la defensa de estos derechos en cualquier parte del mundo hasta que consigamos que sean universales

por la tolerancia y la protección de los derechos humanos y por la memoria de todas aquellas personas que nos precedieron en la defensa de los derechos de la población

punto en primer lugar desde elkarrekin podemos queremos poner en valor el esfuerzo de todos los grupos para llegar a este acuerdo una vez más traemos

en la prevención y erradicación de las violencias machistas un acuerdo ambicioso

estamos muy satisfechas hoy recuperamos la senda necesaria y urgente de abrir la mirada para analizar y comprender mejor la dimensión real de las violencias machistas y además se reforzarán los medios para dar respuestas cada vez

estamos ante un problema de escala mundial que está presente también en euskadi el registro de denuncias aquí sigue creciendo el número y gravedad de los episodios del último mes son alarmantes esta iniciativa trae medidas para el corto

implantar un sistema telemático para reducir los tiempos de respuesta de la policía

para las y los agentes que van a dar esa respuesta se proponen además campañas para la información y sensibilización dirigidas a toda la ciudadanía esta iniciativa también recoge medidas para el medio y largo plazo como son elaborar un diagnóstico sobre todas las violencias machistas

que reúna en una sola hoja de ruta todas las políticas del gobierno en la materia

una iniciativa ambiciosa y que recoge las sensibilidades y propuestas de todos los grupos es muy importante que seamos capaces de avanzar en acuerdos para afrontar

desde luego hay que continuar trabajando y vamos a seguir haciéndolo poniendo este tema en el centro de la agenda de este parlamento

es evidente que la sociedad vasca en su conjunto cada vez está más preocupada y ocupada en denunciar y erradicar esta vulneración de derechos sistemática que sufren las mujeres la ciudadanía con las aportaciones imprescindibles de la teoría y movimientos feministas

para construir una sociedad mejor más justa democrática igualitaria y solidaria y en ese camino estamos comprendiendo que la violencia hacia las mujeres

para que la mitad de la ciudadanía disfrute de una convivencia justa democrática

recortada por ese miedo no se puede con la libertad de ser la que una quiera ser recortada

en definitiva con la violencia como obstáculo para acceder a nuestros derechos fundamentales las mujeres queremos pero no podemos ser ciudadanas de pleno derecho

esfuerzos y recursos para dar pasos más decididos hacia la igualdad real y efectiva hacia una euskadi

lo dijimos el pasado diez de junio de dos mil diecisiete lo reiteramos en octubre también en las comparecencias sobre presupuestos y hoy volvemos a insistir

se ubiquen en el lugar de prioridad que le corresponde en la agenda política del gobierno vasco y de este parlamento

automático no se puede hay que ampliar la mirada tener altura de miras y dar la respuesta que las mujeres vascas necesitan y además demandan

sí pero ya es hora de superar los límites de esa ley la violencia hacia las mujeres es mucho más que la violencia que ejercen parejas y exparejas y en esa línea esperamos que el proyecto de ley comprometido por este gobierno esté a la altura de los tiempos

propuestas para que las instituciones estén a la altura hay una infinidad de formas de ejercer violencia machista hay que nombrarlas hay que visibilizarlas

de lo contrario respondemos a la punta del iceberg ponemos tiritas cuando en realidad lo que necesitamos es una intervención de cirugía de corazón emakunde publica informes anuales cierto pero son muy mejorables para que se acerquen más a la realidad ya que hoy por hoy dejan fuera una parte importantísima de las violencias machistas y por qué creemos que son mejorables son mejorables por dos razones fundamentalmente son informes que se basan en dos fuentes principales

estamos en dos mil dieciocho estudio que tiene siete años y en estos años las mujeres vascas y la ciudadanía vasca

ya que todas tenemos más claro qué es violencia sabemos que solo los golpes no duelen y denunciamos más por lo tanto es un estudio que necesita una revisión este estudio obsoleto se contempla o se complementa mejor dicho con datos de estudio de ámbito estatal y europeo aunque sabemos que las violencias en euskadi

nosotras entendemos que necesitamos datos actualizados de aquí datos de nuestra realidad local la segunda fuente de datos que utiliza emakunde

a partir de las denuncias que registran y sobre los datos que publica la ertzaintza repetimos lo que hemos planteado ya en otras ocasiones primero no todas las mujeres denuncian en sede policial hay mujeres que comunican la violencia a la trabajadora social

a la maestra de sus hijas y nunca llegan a denunciar ante la policía toda esa violencia que es atendida desde los servicios sociales de salud de la educación etcétera

revise su sistema de recogida de datos y la forma de publicarlos

y además esto lo admitió la propia consejera de seguridad en su comparecencia bajo la categoría de lesiones

en violencia intrafamiliar se mezclan denuncias de violencia en el hogar de características muy diversas

por parte de un desconocido o el feminicidio de una mujer con la que no haya vínculo familiar

y esperamos que se mejoren a partir de la iniciativa que presentamos hoy aquí y con la que alcanzamos un acuerdo de todos los grupos en definitiva

sí pero en la actualidad son parciales obsoletos en algunos datos y en consecuencia insuficientes para conocer la verdadera dimensión

por eso se propone un diagnóstico actualizado integral y transversal es decir en el que se involucren todos los departamentos y políticas sectoriales del gobierno vasco

y después del diagnóstico qué pues desgraciadamente seguramente nos tendremos que echar las manos a la cabeza porque nos asustaremos de los datos que se recogen en él pero lo que

y elaborar una estrategia una estrategia de gobierno que comprometa claramente

con objetivos con metas con indicadores con plazos con responsables y presupuestos vinculados y estas medidas

y como no vamos a erradicar las violencias machistas desgraciadamente mañana mismo en el mientras tanto tenemos que continuar dando respuesta a lo inmediato mejorar la atención y agilizar los tiempos de intervención por eso esta iniciativa propone poner en marcha herramientas o dispositivos telemáticos como la app que ya se utiliza en algunos municipios vascos para la conexión

de esta manera la buena práctica de los municipios que han sido pioneros se podría extender a todo el territorio el diseño del dispositivo tiene que ir acompañado del diseño de un protocolo para que la ertzaintza

tenga claro cuáles son los procedimientos de intervención obviamente una herramienta y un nuevo protocolo

a las y los agentes todo esto está recogido la iniciativa una iniciativa como decía al principio ambiciosa y muy completa y por supuesto todos todos todos los procesos deben contar la participación del movimiento y asociaciones de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas

el trabajo y la buena disposición de todas las que hemos participado en este acuerdo tan completo y ambicioso eskerrik asko eskerrik asko arana

sobre violencia de género las políticas que hay que poner en marcha es un paso más para nosotros es importante incidir y ya lo hemos hecho aquí en las sucesivas intervenciones que tenemos en relación

en aspectos como la sensibilización prevención intervención y en este sentido le ponemos nuevamente deberes al gobierno vasco en relación a que se recoja en un diagnóstico profundo y trasversal

machistas como se ha dicho aquí tenemos mucha información pero muchas veces esta información está un tanto dispersa en documentos informes planes y lo que sí conviene es tener una radiografía que contemple todas esas informaciones que tenemos en relación a este tema

en relación a los ámbitos que hablábamos es importante la sensibilización prevención e intervención

recogemos un aspecto en esta transacción que es reducir los tiempos de intervención también con la posibilidad de poner en marcha dispositivos telemáticos concretos y también bueno pues elaborar e implantar protocolos

los correspondientes dispositivos otro de los aspectos que también se contemplan en esa transacción y que también nosotros

de relevancia cada vez que hablamos de este tema es dar una atención personalizada a las mujeres víctimas de violencia de género de maltrato no solo a las mujeres sino también algo que he puesto de manifiesto en mi primera intervención tener en cuenta a los menores que sufren también situaciones de maltrato de maltrato doméstico y que también muchas veces

por estas situaciones finalmente se ha recogido una de las reivindicaciones que nosotros planteamos en todas las iniciativas que debatimos sobre este asunto que es que el gobierno vasco instemos de nuevo al gobierno vasco a la remisión de un proyecto de ley el proyecto de ley comprometido en relación de la erradicación de la violencia de género

y yo creo que felicitarnos todos por el acuerdo y las incorporaciones que de alguna forma se han recogido

todas las que hemos propuesto los diferentes grupos en las diferentes enmiendas y en ese sentido satisfacción y esperar que el gobierno estaremos vigilantes como siempre décimos a que cumpla las

machistas cada día llega a este parlamento y es verdad que forma parte de los temas que más protagonismo tienen en la agenda política desde luego del gobierno vasco

y otras veces porque desde el gobierno se desarrollan informes planes y esas estrategias integrales que hoy se nos pedía a través de esta iniciativa que nos traía elkarrekin podemos desde luego compartimos el diagnostico los datos son preocupantes y nos deben además de preocupar ocupar a este gobierno para que efectivamente seamos capaces

acabar con esta lacra que nos preocupa a todos como he dicho compartimos que este asunto forme parte de la primera línea política y además creo que es así y unido a esto

de las partidas presupuestarias que hagan posible que las políticas puedan llevarse a cabo yo entiendo que en esto estamos todos de acuerdo esta iniciativa que nos traía la señora arana tenía

aplicación móvil que comenzó a hablarse en el ayuntamiento de durango y que luego eudel empezó a trabajar por demanda de otros ayuntamientos entendiendo que debían de dar servicio de una forma más general a todos los ayuntamientos efectivamente el acuerdo al que hemos llegado es un acuerdo unánime y del que desde luego el grupo socialista se felicita creo que

incidido en unas cosas y otros en otras y desde luego para el grupo socialista el desarrollo de la aplicación nos parece algo importante las nuevas tecnologías están para dar servicios

tomando en cuenta las aplicaciones que ya se desarrollan en el resto de españa pues probablemente podíamos ayudar o podremos ayudar seguramente en un espacio pequeño de tiempo a que el tema de las violencias machistas se pueda atajar de otra manera

pamplona el seis de julio de dos mil diecisiete puso en marcha esa aplicación y además la completó mucho más de las que había

en marcha y entendemos que fue en durango donde nace esa aplicación y a partir de ahí es como se empieza a desarrollar

diferentes situaciones y que esa ubicación pueda ser compartida también de una forma inmediata creemos teniendo en cuenta la enmienda que hemos firmado y que vamos a votar que es necesaria la actualización de los datos porque datos hoy y muchos desde luego emakunde ha hecho un trabajo importante en el desarrollo informes y en la actualización de muchas de las situaciones que se le ha venido demandando es importante que todos los informes que existen se recojan se actualicen y se haga de todo ello

integral que nos planteaba elkarrekin podemos para efectivamente de una forma transversal todos los departamentos del gobierno vasco puedan aportar lo que en sus políticas les compete además de eso es importante adaptar las herramientas que ya existen a la realidad actual

la aplicación de móvil y como he dicho al comienzo de mi intervención el asumir compromisos económicos tal y como hablábamos aquel día en el pacto de estado ayer mismo asistimos a las concentraciones que exigían el cumplimiento del pacto de estado y que hablaba un poco

en las últimas semanas en el parlamento vasco por tanto entendemos que el acuerdo alcanzado es importante es importante primero porque lo hemos firmado todos los grupos parlamentarios y es

a señalar teniendo en cuenta que no solemos hacerlo en caso ningún tema compartíamos como decíamos el hecho de que los diagnósticos sean transversales y profundos pero desde el grupo socialista entendemos que diagnósticos se hacen muchos

que hay que ir un poco más allá y por eso nos parecía importante y nos parece importante que en este primer punto se recoja un plazo concreto para que este parlamento

informes que se van a hacer compartimos el tema de los protocolos de intervención y las campañas informativas que se hacen

y el hecho de recoger que le proyecto de ley sobre violencias machistas se traiga cumpliendo los compromisos que adquirió el gobierno

felicitarnos por el acuerdo alcanzado pero teniendo en cuenta que la

primer objetivo la aplicación móvil sí reconocer que estamos seguros que el gobierno vasco el departamento de interior la va a desarrollar y a ver si más pronto que tarde podemos

planteaba aquella de durango y que desde luego nos han copiado en el resto de españa nada más y muchas gracias eskerrik asko rojo

prebenitzea aprovechar la tecnología como herramienta disuasoria contra las agresiones sexuales como herramienta de prevención

para reducir los tiempos y mejorar la atención en las situaciones donde surjan esas violencias machistas esas agresiones la aplicación móvil puesta en marcha

permite enviar a la policía local la geolocalización en caso de riesgo de agresión sexual no se ha hablado del tema pero sí me parece interesante explicar a grandes rasgos cómo funcionan no son exactamente iguales pero son similares

de una forma sencilla para dar el aviso evitando tener que teclear números en situaciones

las personas usuarias en el momento de utilizar ese sistema además existe el botón de

y también existe otro botón como estoy siendo testigo de una agresión

el trayecto de vuelta a casa entonces de manera que si se produce un cambio en el recorrido cualquier familiar amigo amiga que estuviera pendiente pues pueden llamar también a la policía o pudiera dar aviso beraz

egitea el primer punto del texto transado entre los grupos dice recoger en un diagnóstico profundo y transversal la incidencia y prevalencia de las violencias machistas contando con los informes estudios y planes actualizados existentes

así como con los trabajos que se vienen realizando en euskadi en materia de prevención y erradicación de las violencias machistas a fin de visualizar una estrategia integral y objetivos que disponga de los recursos necesarios y presentarlo en el parlamento en el primer semestre del dos mil diecinueve

en este espacio que es el segundo acuerdo interinstitucional porque a veces me parece que no sabemos muy bien cómo funciona o cuál es

de este acuerdo este acuerdo se crea el primero se crea en el año dos mil uno y en el año dos mil nueve se suscribe el segundo acuerdo derivadas fundamentalmente de modificaciones

adoptados este segundo acuerdo recoge compromisos adquiridos por diferentes instituciones firmantes y los protocolos de actuación para los diferentes ámbitos de intervención

eudel y también colegios de abogados abogadas así como fiscalía o el

que podrá ser desarrollado concretado y adecuado en función de los diferentes ámbitos de intervención

eudel viene de hacer un trabajo previo con una alta participación a nivel asociativo también y a nivel técnico

cada año la comisión de seguimiento del acuerdo interinstitucional aprueba un informe de seguimiento y evaluación en el que se recogen por un lado las acciones que cada institución lleva a cabo durante el ejercicio en aplicación del acuerdo y por otro la valoración que dichas instituciones hacen en relación al grado de cumplimiento del protocolo de actuación previsto en el acuerdo por qué debo incidir es que es muy importante porque si empezamos a enumerar los planes programas instituciones espacios creados que decíamos que hay que recoger y visualizar parece que solo con el título o con un enunciado queda pobre y no es así porque cada uno de ellos se desarrolla de un modo

y aun así estos espacios que acabo de mencionar no serían la estrategia en sí la estrategia de la que estamos hablando a la cual apelamos en el punto uno de la transaccional y ante la pregunta yo suelo hacer

la pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina una vez recibí una respuesta interesante que si se cree en la teoría creacionista evidentemente la gallina fue primero y si se cree

en euskadi no puedo evitar hacer un símil con estas teorías mencionadas porque estábamos tratando de concretar cuál era el punto importante el debate central en la iniciativa de hoy

está colgada en la web dónde la podemos recoger dónde la podemos descargar y

la respuesta a la pregunta del huevo y la gallina y las dos teorías y nosotras para dar respuesta a esta cuestión

evolucionista cuál es la estrategia en euskadi en políticas de igualdad pues viene trabajándose y fijándose desde mucho tiempo atrás en todo momento adaptándose a las nuevas situaciones y necesidades renovándose formándose y dando pasos firmes

ampliándose cada vez en ámbitos más diferentes si bien es cierto
que podemos hablar de un hito que marcó un antes y un después y es la ley para la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en euskadi amaitzen joan mesedez bai presidente anderea

de ruta no me gustaría terminar

espacios importantes que creemos que vienen a completar por tanto voy a dejar aquí

a mí me gustaría decir que no nos engañemos y que

que el gobierno actual está con un piloto automático puesto y

a marcarle el ritmo y a decirle una vez más que tiene que cambiar de políticas porque las políticas que están desarrollando y los recursos que se están

están implementando a estas iniciativas no son suficientes porque siguen desgraciadamente muriendo asesinadas muchísimas mujeres y seguimos

muchas mujeres no pudiendo acudir a la calle libres yo creo que es importante y no nos engañemos que ni eudel recoge el sentir mayoritario de las mujeres de euskadi ni del movimiento feminista

interinstitucional al que usted hace referencia tiene una representación mayoritaria de mujeres

el sentir repito mayoritario de las mujeres y lo que el ocho de marzo dijeron en las calles masivamente más presupuesto más recursos para
abolir y atajar las desigualdades que sufrimos las mujeres en euskadi nada más eskerrik asko arana

me gustaría seguir con mi intervención porque me había dejado en el tintero muchas cosas que me gustarían mencionar

qué equivocada está usted no había mencionado en mi intervención que ya venía mencionando puntos y espacios muy importantes por ejemplo los planes de igualdad que se aprobaron en el seno del consejo de dirección de emakunde que marcan las líneas estratégicas de actuación y fijan el recorrido a caminar en el plazo de cuatro años el plazo es medio corto para que puedan ser más inmediatos el séptimo plan de igualdad correspondiente a la once legislatura se presentará

si así procede se aprobará la semana que viene en el consejo de dirección

usted sabe cómo se elaboran estos planes de igualdad usted conoce no existe en ninguna institución un proceso participativo de tal calado no existe si no me lo dice usted no existe dígamelo

en qué otra institución en qué otra administración en qué otra comunidad se elabora un plan de igualdad con esos niveles

no existe no solamente participación por parte de agentes de movimientos asociativos donde efectivamente el movimiento feminista tiene una parte importante

con diferentes hombre por supuesto no todo depende del movimiento feminista hay otro tipo de movimientos que también tienen su espacio por supuesto por supuesto que sí

sabe que es así sabe que es así y es que incluso el proprio lehendakari

dio cuenta dio cuenta de cuáles habían sido los procesos y las líneas de trabajo que se habían puesto en marcha desde un enfoque participativo

contando con participación política técnica social ciudadana con un contracte a nivel técnico que se ha realizado con el personal técnico de igualdad de las distintas administraciones a nivel autonómico foral y local el contraste con el movimiento asociativo de mujeres

el contraste y la recogida de aportaciones se ha realizado a través de una consulta pública

usted conoce algún otro lugar otra administración isiltasuna

no existe por tanto el tema de la no participación no es excusa y este es un hito y estos planes de igualdad son quienes marcan y son parte importante de esta estrategia si a esto se le suman los informes los planes los protocolos los datos los programas porque se hace mención

que es lo mínimo porque el resto el resto el resto de informes de los últimos años que están publicados en la web de emakunde hacen referencia a los últimos datos

y al dieciséis en diferentes y a dos mil dieciséis mesedez

el porqué pues porque de probablemente desde eustat no haya datos oficiales para poder hacer contrastes oficiales al respeto pero con los que no son oficiales

de las instituciones nos queda la sensación y que puede ser que algún dato

de todos los informes que están allí colgados y que están a disposición de todos nosotros y nosotras

es uno de los informes y aun así tiene razón lo que está

y es lo que estamos pidiendo en la transaccional porque es necesario por supuesto

por tanto como venía diciendo

todos estos trabajos tienen un recorrido haciendo otra vez alusión a esa teoría de la evolución

está constantemente en cambio y mejora por supuesto margen de mejora siempre pero no me diga que las mujeres están siendo asesinadas en este país por falta de presupuesto lo único que cuenta es el dinero

le vuelvo a decir todo esto que le acabo de enumerar en mis dos intervenciones

de trabajar en euskadi en relación con las políticas de igualdad es esa es transversal es transversal es transversal porque están los ayuntamientos están las diputaciones están las ayudas movimientos asociativo está gobierno vasco están los diferentes departamentos

trabajan trabajan a una en este tema por tanto no me diga que solo es un tema de financiación y de marcar en una casilla tanto mil más

un diagnóstico fijo para que todas y todos seamos conscientes por tanto entiendo que aunque hayamos tenido

entiendo que la transaccional es buena entiendo que es un acuerdo bueno y sí que quiero agradecer a todos los grupos pues esa capacidad que hemos tenido también efectivamente dejar pelos en la gatera de poder llegar a este punto

edo indarkeria mota oro baztertzen du hiru el parlamento vasco manifiesta su preocupación porque al menos se han registrado treinta y dos denuncias por delitos y discursos de odio con motivo de orientación sexual o identidad de género que representan el veinticinco por ciento de todos los casos según los últimos datos facilitados por el departamento de seguridad y denuncia públicamente que esta violencia es el resultado de la desigualdad y discriminación estructural

que ha realizado nuestra sociedad lau el parlamento continuará impulsando medidas para remover todos los obstáculos existentes para el ejercicio real y efectivo de derechos y para la prevención y erradicación de toda forma de violencia

fóbica en todos los ámbitos de la sociedad bost el parlamento vasco manifiesta su condena a las leyes procedimientos o medidas que por acción u omisión discriminen o criminalicen a las personas por motivos de orientación sexual

de los derechos humanos en cualquier parte del mundo sei eusko legebiltzarrak europar batasunari

declaración institucional de rechazo ante el ataque de israel contra el pueblo palestino estas últimas semanas el pueblo palestino ha marchado con motivo de la conmemoración del setenta aniversario

el catorce de mayo la represión hacia esta protesta pacífica por parte de israel

heridas la mitad de estas heridas lo han sido por munición real y ciento treinta personas se encuentra en estado crítico según unrwa

y solo les queda combustible para continuar con las operaciones para siete días ante este ataque el parlamento vasco bat

contra miles de palestinos que marchaban para protestar por el traslado de la embajada de estados unidos a jerusalén y cuyo resultado ha sido la muerte de cincuenta y nueve personas y más de un millar de heridos

episodios más sangrientos en los territorios ocupados desde el año dos mil catorce asimismo el parlamento vasco solicita al estado de israel que garantice el respeto a los derechos humanos del pueblo bi traslada sus condolencias y su solidaridad a todas las personas directa e indirectamente afectadas hiru

junto a la unión europea y a una gran parte de la comunidad internacional

tras el sangriento balance de víctimas causados por el ejército israelí ante las protestas palestinas

que provoque más víctimas entre la población civil eta lau reafirma el acuerdo del congreso de los diputados de veintiséis de noviembre del dos mil catorce sobre el reconocimiento